que son en realidad a mi modo de entender hipótesis de trabajo sobre las cuales el gobierno vasco no tiene por costumbre pronunciarse

ratifico en cualquier caso no me podrá negar en cualquier caso insisto que hemos mantenido siempre la misma posición institucional

por un lado nuestro máximo respeto a las decisiones soberanas de las cajas de ahorro vascas dado que a ellas y solo a ellas

que mejor entiende que se ajustan a su actividad y a su evolución y a sus posicionamientos futuros

que nos otorga la legislación vasca con la mirada puesta

y ahora además para que la participación en kutxabank se gestione convenientemente

mi preocupación y me reafirmo en lo dicho públicamente esto es en ello está la discusión pero no solamente la discusión tengo la firme

de que no es aceptable la consideración de concertación para las cajas de ahorros vascas como también o como pueda pretender el banco de españa como también es

de que se decida definitivamente y se aclare a quién afecta el posible fondo de reserva beraz mario fernándezen esaldi batzuk aipatzen dizkidazu nire

le merecen el máximo respeto institucional los acuerdos adoptados válidamente por los órganos de una entidad bancaria como kutxabank usted ha hecho referencia e incluso a un posible modelo diferente que pudiera seguir kutxabank en relación a otros modelos que existen yo

se quería referir al caso de caixabank por ejemplo o no tiene por qué ser el modelo de cualquier otra entidad bancaria debe ser el modelo de gestión específico

estas decisiones por lo tanto señor isasi no los vamos a adoptar ni usted ni yo porque se van a adoptar insisto en los órganos de decisión de la entidad es decir

y tal y como han decidido recientemente recurrir las nuevas directrices del banco de españa una decisión y un recurso que respaldamos y

tengo no solamente la preocupación sino además tengo la esperanza de que se resuelva satisfactoriamente en cualquier caso esta es su responsabilidad e insisto

en estos órganos de las cajas han merecido y merecen todo nuestro respeto

lo reitero el arraigo la obra social el compromiso son las empresas y la economía vasca y la toma de las decisiones aquí en euskadi en este marco el gobierno va a seguir desarrollando su labor como absoluto respeto y con absoluta responsabilidad

de la que son dueñas y por otra parte responsabilidad en las facultades de supervisión y control

lo que está en nuestra mano para promoversoluciones humanitarias y lo sabe usted bien en base a las posibilidades que permite el marco legal que las permite la mayor parte de las veces lo hacemos

seguimos de cerca la evolución de este preso y mantenemos las gestiones y mantenemos también los contactos necesarios para tratar de mejorar su situación lo antes posible por las diversas vías que usted conoce bien y que sabe también que este gobierno

hitz egin nahi badugu zerga erreformaz egin dezagun pasen de una vez de las palabras a los hechos hagamos una verdadera reforma fiscal una reforma fiscal profunda

un sistema fiscal justo y redistributivo que nos permita sostener y desarrollar un estado de bienestar que responda realmente a las necesidades de la ciudadanía escuchen escuchen a los agentes sociales a las ongs que demandan reformas profundas del sistema fiscal

son claras señor consejero un sistema fiscal que sostenga una sociedad igualitaria que no ponga en cuestión los derechos sociales en momentos de dificultad económica

no nos hagamos trampas al solitario poniendo parches de cara a la galería

sobre capital y un nuevo impuesto sobre qué cuál es el objeto de ese nuevo impuesto miren si quieren abordar reformas fiscales en profundidad avancen avancen de una vez pero en serio y no como hasta ahora aclárense porque señor consejero no se puede estar en misa y replicando

señor lehendakari la pobreza energética afecta a día de hoy en euskadi a un diez por ciento de la población

los gobiernos debieran garantizar el acceso a suministros básicos y se debe garantizar que no se produzca ningún corte de suministro a las personas con situación de vulnerabilidad

a parte del informe que el gobierno trajo en el último momento sin posibilidad de contraste contábamos ya con estudios de quienes están a pie de calle los que nos hablan de ciento trece mil personas en euskadi en situación de pobreza

es decir un sexto de la población vasca con dificultades para atender sus necesidades básicas incluidas las energéticas en su hogar o con riesgo real de no poder pagar las facturas

esa realidad y la llegada de un nuevo invierno nos hace volver a plantear lo que aprobamos en febrero y le hemos venido planteando varias veces más desde entonces

por dificultades económicas sobrevenidas eskerrik asko

cada vez que se nos pregunta o se nos interpela por esta cuestión

incide más en pedir al gobierno vasco que actúe de forma subsidiaria

que en pedir realmente al propio reino de españa que modifique sus políticas

la proposición no de ley aprobada por el parlamento vasco insta de manera prioritaria al gobierno del reino de españa para que articule las medidas que posibiliten el mantenimiento de los servicios energéticos a las familias con dificultades

al gobierno vasco se le insta de manera subsidiaria entrecomillado en tanto el gobierno de españa no asuma esta responsabilidad es decir con un límite temporal

y en el ejercicio de su capacidad de autogobierno sin hacer mención a qué recursos se prevé destinar a este fin en relación a este tema hemos insistido en muchas ocasiones en que la pobreza energética igual que la alimentaria

son una expresión más de una realidad hay familias que sufren situaciones

hay familias pobres y como consecuencia de eso situaciones diferentes de pobreza y la ausencia de recursos se manifiesta en problemas para atender todas las necesidades todas ellas también las básicas tal y como aprobó el parlamento en una resolución del pasado viernes que hacía referencia a la situación de pobreza general

en euskadi a diferencia del reino de españa que era el principal interpelado

de la pcv y de las ayudas de emergencia social eskerrik asko aburto jauna

gracias presidenta señor aburto en noviembre de dos mil trece su partido coincidió en el congreso de los diputados en el reino de españa como usted le llama en la necesidad de un protocolo claro para proteger a las personas vulnerables ante la pobreza energética

ustedes no tienen ningún tipo de decoro en pretender llevar los acuerdos de la cámara al cajón de los olvidos la resolución a la que usted ha hecho mención ahora mismo ustedes votaron en contra porque ustedes tienen un mandato expreso desde hace nueve meses en este parlamento pero ustedes como siempre

ante los ciudadanos vascos ante esos que están pasando dificultades

ustedes siempre fuertes con los débiles y débil con los fuertes como usted sabe o debiera de saber el porcentaje de hogares en el país vasco con gastos de energía doméstica superiores al diez por ciento

en la memoria de la fiscalía que se va a presentar el próximo lunes se recoge una subida de un cuatrocientos por ciento

es decir delitos de quienes toman la energía de forma fraudulenta demostrado está que un altísimo porcentaje de ese cuatrocientos por ciento responde a quienes no pueden hacer frente a esa necesidad esencial pero que quieren y desean calentar sus casas y el pnv una vez más

dice que en el invierno será posible volver a recortar el suministro a las familias vulnerables

ustedes debieron afrontar este problema y dejar de dedicarse a la política del titular estamos ante un gravísimo problema que tiene nombres y apellidos

opción de la derecha venga de donde venga del reino de españa como usted le llama o de la derecha

los socialistas creemos que es preciso que se legisle para que el suministro de energía sea un derecho social básico que los consumidores vulnerables a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado y lo más importante que no haya cortes de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza energética

creemos que el gobierno vasco puede actuar para que aunque sea por mediación para impedir que a ningún ciudadano le corten la luz o el agua porque no pueda afrontar la factura los hay

urge que atiendan lo que les décimos no nos urge a los socialistas

y a ustedes les da esto exactamente igual eskerrik asko

parece que alguien olvida sus responsabilidades recientes de gobierno donde parecía que este problema

en cuatro años no fueron capaces de hacer nada y ahora se nos exige mire tenemos el sistema el mejor sistema de protección social del estado

sería bueno aceptar esa realidad yo cuando habla de la derecha

me comparo tranquilamente con usted soy capaz de mirarle a los ojos y de ver

y qué partido realiza políticas más o menos sociales disponemos de un sistema en este país de renta de garantía de ingresos y de prestación complementaria de vivienda

básicas de las familias que disponen de pocos o de ningún recurso necesidades entre las que se incluyen también

las ayudas de emergencia social vienen a cubrir de manera más específica aún esta demanda ayudas de emergencia social que este gobierno ha incrementado en cada uno de los ejercicios no como hizo el anterior en los dos últimos de hecho durante la crisis económica

que el aumento de la demanda de ayudas de emergencia social

hipotecas alquileres consumos de energía nuestra apuesta la apuesta de este gobierno sigue ser la de seguir siendo fuertes con los débiles fuertes

y débiles con los fuertes fuertes con los débiles con aquellos que peor lo pasan con aquellos que tienen más necesidad

se está convirtiendo en una quimera porque ya empezamos a dudar que pueda llegar a existir realmente nosotros podemos compartir y compartimos la dificultad de elaborarla por lo que supuso integrar en su seno tres organizaciones distintas pero su actividad arrancó en el año dos mil diez

paralelamente se le dio un plazo de cuatro meses para hacerla muchos han sido los requerimientos desde entonces pero tres años después de eso y llevando ustedes dos ya en el gobierno la dificultad debe de ser extrema porque casi finalizado el dos mil catorce

los problemas que generaba para lanbide la ausencia de una rpt la necesidad de que se contase con ella en el más breve plazo de tiempo posible y que la redacción de la misma no le competía a él sino que era responsabilidad de su departamento señor erkoreka usted en mayo

como suele decirse unos por otros la casa sin barrer como decía usted señor consejero en mayo de este año compareció para decir que lo había dicho el señor agurto que en el mes de julio lanbide iba a tener rpt no iba a ser posible que no era cierto

porque junio paso y la rpt sin llegar pero es que pasó junio julio agosto septiembre octubre

llegará por navidad porque usted dijo señor erkoreka en esa comparecencia

reconociendo como reconoce la importancia de la rpt para el buen funcionamiento de lanbide no es de recibo que esta todavía no este elaborada le reconozco la habilidad señor erkoreka

no es de recibo que alguien que cuando se trata de reclamar la actuación de otras administraciones es absolutamente exigente sin embargo con relación a la actuación de su departamento es absolutamente benévolo y solo dice que la aprobará a la mayor brevedad y que es brevedad

porque eso lo dijo en mayo estamos en noviembre y sigue sin llegar

el señor aburto o que si se mete por lo menos nos conteste porque

cuanto falta puede dar una fecha concreta eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora llanos efectivamente como usted hace notar el mes de mayo comparecí en la comisión de políticas sociales para hablar sobre este particular usted no estuvo allí pero veo que ha leído el acta pero la ha leído mal la ha leído incompleta muy sesgada porque

exactamente los trámites que era imprescindible superar todavía para que la rpt pudiera culminarse cuando me dijeron

en el tiempo no lo puedo cifrar porque no se de antemano si entre las alegaciones que pueden hacer y tienen derecho ha hacer y yo no puedo omitir ese trámite

y hay que responderlas individualizadamente una por una bueno ahora ya sabemos que son quinientos treinta y nueve ahora ya sabemos

están siendo analizadas por lanbide conjuntamente con la dirección de función pública y que van a ser respondidas a partir

individualizadamente eso libera en parte el camino y a partir de ahí

faltan todavía y si usted me puede identificar algún trámite

me lo explica por favor porque la misión del departamento de administración pública en la elaboración del proyecto de rpt de lanbide consiste en encuadrar la propuesta organizativa de lanbide en el marco de los presupuestos de la función pública seguro que sabe es muy procedimentalista muy garantista exige garantías exige derecho a alegaciones exige negociaciones no ficticias si no reales con los representantes de los trabajadores

esto inevitablemente se traduce en días en semanas

justificar ahora mismo si quiere y los que tengo que dar se los voy a identificar

pero esos trámites son imprescindibles no los puedo soslayar salvo que usted me exima de alguno de ellos y la cámara cuente con el aval pero corremos siempre el riesgo de que vayan a los tribunales

por tanto no le voy a dar una cifra concreta pero los trámites son

señor erkoreka la rpt sin hacer el señor aburto porque es responsabilidad suya y usted

de la ley es una pena señor erkoreka que no le pueda echar la culpa de la falta de rpt al gobierno central que no descarto que no lo haga en la segunda intervención verdad

o la recentralización del estado pero lo cierto es que a día de hoy lanbide sigue sin relación de puestos de trabajo y porque señor erkoreka por qué no nos puede dar una fecha esa fecha que en otros casos exigen y sin embargo usted no la puede dar el mes pasado

para avanzar con excelencia en los servicios públicos y para motivar e ilusionar pues aplíqueselo señor consejero aplíquenselo

porque lo que está claro es que eficientes no lo son desde luego lanbide tiene mucho

y lo mismo puede aplicarse a la gestión de lanbide mire la gestión voy a utilizar una frase que usted utilizó

dijo que eran desastrosas pues el mismo adjetivo voy a utilizar la gestión de lanbide es desastrosa es desastrosa en la generación del empleo y desastrosa en la gestión de las ayudas sociales y eso es muchas ocasiones ha estado ocupado más en su autorganización que en cumplir lo que debe de ser su objetivo aplíquense

señora llanos que sea precisamente usted la que me diga que el cumplimiento de la ley es una escusa

y si no la cumplimos aquí nos exponemos primero a privar de garantías a los empleados públicos y segundo a que vayan a los tribunales

pero le voy a poner un contraejemplo de lo que no deberíamos hacer en ningún momento este mismo año

dicta una sentencia anulando dos relaciones de puestos de trabajo porque se aprobaron por parte de cospedal seguro que les suena quién es cospedal las aprobaron sin negociar con los sindicatos se sentaron con ellos pero la negociación fue un paripé y el tribunal efectivamente

aquí no se ha cumplido el trámite como es debido no se ha invertido en esto el tiempo que había que

anulamos la rpt y obligamos a la administración a que reponga todos los interinos

casi setecientos esto es lo que no quiero que me ocurra aquí

no la he fijado yo y me extraña usted que apele al incumplimiento de la ley o que me pida la insumisión que lo haga eh bildu todavía pero que lo haga usted por favor

zurea da hitza sí gracias señora presidenta señores consejeros señora consejera el fondo europeo agrícola de desarrollo

de financiación que tiene por objeto reforzar la política de desarrollo rural de la unión europea el plan de desarrollo rural dos mil quince dos mil veinte

autónoma este documento es un documento muy importante si nos fijamos en los puntos

liderar ese documento que son fomentar la transformación de conocimiento innovación en el sector agrario forestal en el medio rural

fomentar la organización de la cadena alimentaria fomentar la inclusión social la reducción de la pobreza el desarrollo económico en las zonas rurales

promover la eficiencia de los recursos naturales presentar o

a una economía baja en carbono del sector agrario alimentario y forestal como pueden ver es un documento muy importante de ejecución para seis años y

de ahí la importancia que tiene para el grupo popular también entiendo que para el gobierno y para toda la comunidad autónoma

comunidad autónoma y es por lo que queremos saber cuáles han sido los criterios que han seguido el gobierno para su aprobación

como usted dice para el gobierno es muy importante junto con el resto de las

a la comunidad autónoma ascienden a ochenta y siete coma uno millónes de euros para este periodo y que las previsiones de gasto público total

por lo que resulta obligado evidentemente focalizar a dónde los vamos a destinar como consecuencia de la coyuntura económica que vivimos se ha optado como estrategia general el priorizar la inclusión de medidas que incidan directamente en la generación de activación económica en la reactivación económica del país y en la generación de empleo

al mercado financiero y garantizando el desarrollo sostenible de todas las zonas rurales del país hay que recordar que además este documento se ha elaborado de forma participativa

y los principales agentes que interactúan en el medio rural y se han agrupado en cinco grupos técnicos el texto resultante el acordado entre todos fue enviado a la comunidad europea el pasado veinticuatro de julio por cierto la única comunidad que lo hizo en tiempo y forma

de la comisión europea y se están volviendo a analizar por parte de todas las instituciones que han formado parte de los grupos de trabajo señalando las principales líneas analizándolas concretamente voy a señalar algunas de ellas las que consideramos básicas

a la instalación del colectivo de jóvenes agricultores que asciende a un tres coma siete de los fondos feader la dotación de fondos feader un dos por ciento para el ámbito de la transferencia de conocimiento el impulso con carácter prioritario a la producción ecológica y el apoyo a la promoción de determinados distintivos de calidad el desarrollo de empresas agrarias destinándose el tres coma siete de los fondos de los que el treinta y uno por ciento corresponden a instrumentos financieros la selvicultura a

los pagos a las personas agricultoras de zonas de montaña u otras zonas con limitaciones específicas por lo que respecta al programa denominado leader se reserva el nueve coma ocho de la dotación de los fondos feader

extensión de las actuaciones en la articulación de la política de desarrollo rural en toda la comunidad autónoma

de los fondos comunitarios estas son las principales líneas de actuación que se han acordado insisto entre gobierno diputaciones forales y todos los agentes implicados

señora consejera usted sabe debe saber que esta cámara aprobó en abril de mil novecientos noventa y ocho la ley de desarrollo rural

articular los instrumentos necesarios que permitan la proyección coordinada de las políticas sectoriales que afectan al medio rural

o productivos con este objetivo el artículo nueve de la ley se crea landaberri como órgano de colaboración y coordinación interinstitucional en materia de desarrollo rural y en su seno se produce la colaboración y coordinación necesarias para la aplicación de la ley el artículo diez

y la primera función es informar las propuestas de programa de desarrollo rural previamente a su aprobación en el segundo punto habla de qué otros planes y proyectos deben ser aprobados por landaberri previamente además esta ley tiene un anexo donde se enumeran los treinta y tres planes sectoriales que deben ser informados por landaberri y además añade sin prejuicio de otros que puedan afectar en mayor o menor medida

y si vamos al anexo dos podemos ver que el primer punto es plan estratégico rural vasco como usted ha dicho

tan importante como el gobierno vasco y las diputaciones son los municipios y es en landaberri donde se conjugan esos tres niveles de la administración

y creo que no se ha cumplido la ley en este caso y que

que su departamento y el gobierno no está pasando por landaberri pero eso será punto para hablar en otro momento de landaberri pero es que nos parece muy grave que el

no pase por landaberri porque si el objetivo básico

confluyan en un punto de encuentro donde sea se debatan

acuerden aquellas políticas que se van a poner al servicio del medio rural me sorprende que usted no haya cumplido con la ley en este caso y no haya pasado este documento por landaberri además hay otro incumplimiento su grupo político

señora lópez de ocariz es cierto que

de desarrollo rural se tiene que llevar a cabo la implementación entre todos los agentes pero la apuesta en marcha del plan ha contado con todos aquellos agentes que tienen competencias

entendemos que se ha seguido todo el procedimiento y aún queda por hacer todas las alegaciones definitivas a lo que la comisión europea nos ha observado

es el momento en el que antes de enviar la decisión definitiva y el programa definitivo a la unión europea se puede pasar por landaberri y se puede analizar y es ahí donde se llevará a cabo la implantación es cierto pero inicialmente tiene que ser considerado allá donde los órganos competentes tienen esas competencias tanto

como de puesta en marcha de ese plan de desarrollo rural eskerrik asko

señor consejero han transcurrido ya quince años desde que las primeras adjudicaciones de contratos de alquiler de las viviendas de protección oficial en benta berri en donosti san sebastián estas viviendas corresponden a una promoción de quinientos diez viviendas protegidas en régimen de alquiler ejecutadas por el gobierno vasco

en el que se hace una operación con los terrenos donde se construyeron las viviendas objeto de esta interpelación y que pertenecían parte al ayuntamiento de san sebastián parte al gobierno vasco y una parte mínima al estado y es en ese año mil novecientos noventa y dos cuando se firma un acuerdo entre el ayuntamiento de donosti y el gobierno vasco por el que se le cedían a este las parcelas

dichas propuestas se traducen como décimos en quinientos diez viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en las que en el año mil novecientos noventa y ocho empiezan

dichas viviendas son publicitadas como un logro del departamento de ordenación del territorio vivienda y medio ambiente en el año mil novecientos noventa y cuatro se acuerda adjudicar como decía a través de un concurso público a una ute formada por metrovacesa y valle hermoso la promoción y construcción de estas viviendas

en el protocolo de actuación entre el departamento de vivienda y asuntos sociales del gobierno vasco y la

que el alquiler tendrá un plazo de duración de doce años desde la entrega del folleto hasta la firma de los contratos el gobierno vasco desaparece los primeros contratos de alquiler se firman como decía antes a finales del año mil novecientos noventa y ocho y ya desde entonces

empiezan los problemas al recibir el borrador del contrato descubren que esa opción de compra que estaba publicitada no aparece en el borrador y se sienten engañados

los vecinos afectados forman una asociación alokairu que tiene contactos con el gobierno vasco sucesivos contactos pero que nunca lo que no han tenido es soluciones o por lo menos no todas las soluciones que demandaban desde los años mil novecientos noventa y ocho mil novecientos noventa y nueve esos

en las viviendas de protección oficial se encuentran en una situación de incertidumbre

preferente de compra de las mismas posibilidad que luego no se materializó e incertidumbre porque los distintos gobiernos como decía también no le han aportado soluciones terminan las dos legislaturas en la que la responsabilidad correspondió al consejero madrazo

no apareció se hizo sí una propuesta de resolución dicha propuesta consistía en que se adaptaba la promoción a la tipología de vivienda de protección pública entre las existentes en ese momento que pasaban a contar con una calificación de vivienda de protección pública permanente y así se conseguía rescatar dicha promoción para el interés público sin embargo

a finales de dos mil diez se cumplían los doce años de arrendamiento y las condiciones de su contrato pasarían a ser renovadas de año en año hasta el año dos mil veintiocho

de prórrogas por cinco años y a partir de ese momento de prórrogas de un año la realidad es que

y lo que es peor no saben lo que va a ocurrir en los próximos años padecen una indefinición sobre el futuro de sus viviendas y están lastrados además porque los alquileres exceden

porque sí señor consejero a la incertidumbre hay que unir que los alquileres que pagan son superiores a los de una vivienda de protección oficial como digo

es que si tienen necesidad de una vivienda más grande o de cambiarse a otra más pequeña no lo pueden hacer

porque sus necesidades familiares sus circunstancias familiares han cambiado y han aumentado y no pueden acceder a estas viviendas más grandes y también existen por otro lado personas

sus viviendas se le han quedado muy grande necesitan viviendas más pequeñas y por las que pagar alquileres menores pero tampoco les está permitido cambiarse y tampoco pueden renunciar a esa vivienda y solicitar una de etxebide

quedarse sin vivienda como le he relatado el gobierno vasco les viene realizando distintas promesas desde hace tiempo pero que nunca se ven satisfechas

llegarse a una solución hace unos meses nos reunimos con su departamento y este se comprometió a reunirse con los vecinos y con la ute en benta berri para buscar soluciones

con la ute pero quisiéramos saber que nos detallara cuál es el contenido de estas reuniones a qué se han comprometido exactamente pero por lo que sabemos la reunión con los vecinos no se ha dado

no se ha reunido con ellos no se ha reunido con ellos para conocer de primera mano sus incertidumbres sus dudas sus problemas sus demandas tampoco

reunión que hemos tenido conocimiento y que queremos que nos detalle aquí tenida con la ute tampoco

que esta ute tiene con respecto a las viviendas ver si de alguna manera pueden despejar la incertidumbre que tienen en este momento o si no la pueden despejar

no está atendiendo al problema como se merece por ello es por lo que nosotros solicitamos esta interpelación porque necesitábamos que nos diera respuesta a las siguientes cuestiones hasta donde sabemos como le decía se han reunido con la ute pero nos gustaría saber cuál es el contenido de esa reunión a qué se ha comprometido la ute qué va a hacer exactamente

si su situación de incertidumbre se va a disipar o si van a tener que estar esperando

entre los inquilinos de las viviendas porque a su departamento le consta y sé que le consta que esas demandas existen que esas peticiones existen también nos gustaría saber señor consejero cuáles son las razones por las que el gobierno vasco

para buscar esas soluciones definitivas para escucharles para ver sus preocupaciones para ver las demandas de más de quinientos familias donostiarras también nos gustaría saber además de por qué no se ha reunido si se piensa reunir a partir de ahora si tiene planificado algún encuentro con los inquilinos de estas viviendas

cuál es la solución exacta que está barajando el gobierno vasco teniendo en cuenta que el quince de noviembre del año que viene vencen los contratos y nos gustaría también cuáles son las razones por las que los inquilinos de esta promoción de vivienda no pueden ser solicitantes en las promociones de etxebide por qué no puedensolicitarlas creo

y su departamento tienen mucho que hacer en este asunto pero que han hecho poco hasta este momento que tienen que implicarse

porque quinientos familias así lo están demandando y necesitando esperamos que nos dé su respuesta y no lo espera solo el grupo popular creo que las familias
de benta berri son las que más lo están esperando eskerrik asko llanos andrea aburto jauna

bai mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok en primer lugar y antes de responder a la cuestión planteada por la señora llanos

que si bien se expone de manera somera en la justificación creo que debe ser destacada nos encontramos ante una promoción privada

de protección oficial en régimen de alquiler situada en donostia por tanto no son viviendas propiedad del gobierno vasco ni tampoco de la sociedad pública

la relación que se produce entre los inquilinos y la empresa es una relación jurídica privada siendo la única intervención del gobierno vasco en la actualidad el visado en su caso de los nuevos contratos de arrendamiento que se produzcan a través del visado

el departamento de empleo y políticas sociales se limita a verificar que las personas que acceden a esas viviendas cumplen con los requisitos de acceso que están determinados en la normativa aplicable sobre viviendas de protección oficial una vez aclarada esta cuestión debemos

y recordar que en su condición de promoción concertada los beneficios de la promoción y de la construcción de las quinientos cuarenta viviendas de protección oficial fueron adjudicadas a la ute formada por las mercantiles tal y como usted ha señalado metrovacesa

de quince de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro en la citada resolución se disponía en cuanto a las condiciones del régimen de alquiler que el plazo de duración de la cesión obligatoria en alquiler de las viviendas

era de doce años asimismo en aquel momento las viviendas de protección oficial tampoco se calificaban de manera permanente

sino que quedaban protegidas por un plazo determinado que en aquel caso en el caso de las viviendas en régimen de alquiler era de treinta años

del decreto trescientos seis barra dos mil de veintiséis de diciembre sobre régimen de viviendas de protección oficial teniendo en cuenta su calificación es importante señalar también que las personas inquilinas tienen que tener presente

son contratos de alquiler de viviendas de protección oficial con una serie de requisitos tanto para poder acceder a las mismas como para calcular sus rentas y esta calificación como viviendas de protección oficial se mantendrá hasta el año dos mil veintiocho año en el que transcurriría el plazo de treinta años

posteriormente a todo esto el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis se firmó un protocolo entre el entonces consejero de ordenación del territorio vivienda y medioambiente y la ute formada por vallehermoso y metrovacesa mediante el que no se modificaba

obligatoria de las viviendas de alquiler así pues el plazo de duración del régimen de alquiler seguía siendo

por lo que transcurrido ese plazo mínimo al termino de los doce años los adjudicatarios vallehermoso y metrovacesa eran libres de continuar gestionando las viviendas

o bien proceder a la venta de las mismas en el protocolo así como en los contratos de arrendamiento se recogía expresamente que los arrendatarios gozarían de los derechos de adquisición preferente establecidos en el artículo veinticinco de arrendamientos urbanos en el ejercicio de ese derecho de adquisición preferente sin embargo hay que tener en cuenta que en todo caso

el derecho de adquisición preferente a favor de nuestra administración de la administración general de la comunidad autónoma del país vasco regulado en la ley siete barra ochenta y ocho

en este punto es importante señalar que estamos hablando de viviendas de protección oficial y por lo tanto los futuros adquirientes de estas viviendas en su caso

o no sean los actuales arrendatarios tendrán en todo caso que reunir los requisitos para ser beneficiarios de viviendas de protección oficial

este es un hecho a mi modo de ver reseñable como sabrán actualmente los requisitos para poder acceder

en régimen de compra son ser mayor de edad estar empadronada o empadronado en un municipio de euskadi carecer de vivienda en propiedad

los dos años anteriores y que aquellas personas que vayan a ser titulares de la vivienda acrediten

que sus ingresos ponderados se sitúan entre

euros de la franja baja y de los treinta y nueve mil de franja

en el contrato de arrendamiento firmado por todos y cada uno de los inquilinos contrato que fue entregado

a todas las personas interesadas para que analizaran su contenido tal y como nosotros hemos tenido ocasión de saber se establecía que el plazo de duración del contrato era de un año

del citado contrato sin embargo para alcanzar la duración mínima de cinco años el contrato se prorrogaría obligatoriamente por otros cuatro años sucesivos salvo que el arrendatario manifestara al arrendador una voluntad diferente una voluntad

además al vencimiento de la cuarta prórroga obligatoria el arrendatario tenía también el derecho de prorrogar el contrato por un plazo de otros cuatros

de un año salvo también que manifestara su voluntad de no renovación

en el año dos mil diez el contrato se prorrogaría de manera tácita por periodos de un año salvo que cualquiera de las partes notificara

de no renovación en este contexto el veintidós de julio de dos mil diez la ute comunicó al departamento competente en materia de vivienda que estaban considerando la posibilidad de proponer a los arrendatarios que tuvieran contrato en vigor

de sus obligaciones contractuales una prórroga de cinco años atendiendo a la voluntad de la ute de continuar con los alquileres los contratos fueron prorrogados cinco años mediante un anexo a los contratos sin necesidad en ese caso de visado

no ha propiciado una solución definitiva a las más de quinientos familias donostiarras que se alojan en las viviendas de protección oficial de benta berri en donostia sin embargo

ha mantenido numerosas conversaciones tanto con la ute benta berri ahora formada por metrovacesa alquileres urbanos y testa residencial como también con los inquilinos de las viviendas la conclusión

es que la ute benta berri ha trasladado al departamento de empleo y políticas sociales que su voluntad su voluntad sigue siendo la de continuar gestionando las viviendas en régimen de arrendamiento esa es la voluntad de benta berri y este gobierno
creemos que debe respetarlo eskerrik asko aburto jauna

gracias de nuevo señora presidenta

que lo compartimos y la respuesta que me

y me la imaginaba porque es la que dio a este grupo por escrito

concretamente el portavoz de este grupo se lo preguntó y además es que textualmente le dijo cosas que hoy aquí también textualmente las ha dicho que estábamos en un contrato privado entre una empresa adjudicataria y los inquilinos que el papel del gobierno vasco

los contratos presentes sin futuros tanto los de alquiler como en su caso los de venta mientras tengan la calificación de viviendas protegidas señalaban en su respuesta eso sí y hoy también lo ha dicho aquí que tienen voluntad de buscar soluciones eso sí en defensa del interés general y dentro del marco legal

exclusivamente aquellas que la ute proponga soluciones usted ha dicho que se ha reunido con los vecinos yo sí me he reunido con los vecinos

y yo sí he hablado con los vecinos esta misma mañana he hablado con el vicepresidente de la plataforma y ellos a mí lo que me trasladan es que no han tenido reuniones con el gobierno vasco

al señalar que si se venden las viviendas los vecinos tienen el derecho de preferente adquisición que además se cuida muy mucho diferenciarlo aunque usted aquí no lo ha hecho del derecho de adquisición preferente porque señalan que cualquier otra solución se opondría a ir en contra de la legalidad vigente aunque hoy aquí ha dicho que lo podrían adquirir el gobierno vasco que tiene un derecho

esa es la solución que plantea que las adquiera el gobierno vasco no porque estaría bien saberlo

y sobre todo que se la exponga a los vecinos porque si han tenido ustedes una relación con la ute si la ute les ha dicho que tiene voluntad de continuar con el arrendamiento

qué seguridad tienen los vecinos van a seguir en la incertidumbre permanente

y esperando que no cambie la voluntad de la ute ese es el papel

esperar a que no cambie de voluntad la ute

al importante que es diseñar la política pensando y centrándoselas a las personas

lo comparto aunque usted ahora nos diga que hacemos el ridículo como dijo usted el otro día en el pleno

ha entrado ya en campaña y la contienda política le puede pero en fin aunque usted no lo crea y aunque usted nos diga que nosotros hacemos el ridículo yo tengo que decirle

nos importan las personas y pensamos en el diseño de la política

dónde dónde quedan los intereses de los vecinos no son personas los vecinos de benta berri yo no sé si

tienen que venir lakua a manifestarse para que les atiendan sus demandas como le decía la única solución que se da desde su departamento

es el cumplimiento de la ley es esperar a la voluntad de la ute esperar a que la voluntad de la ute no cambie

sabía que había personas que querían cambiar de vivienda porque le han dirigido la carta a usted a su departamento y desde su departamento se le ha dicho que no podían cambiar y que no podían estar en etxebide

optar a ese cambio pues mire yo creo

la política está para hacer posibles cosas que en un principio parecen complicadas y a lo mejor como usted dice no tiene la obligación legal de intervenir pero esto ya lo hemos debatido usted y yo en alguna ocasión a lo mejor no tiene obligación legal de intervenir pero sí obligación moral porque la verdad es que si uno piensa en las personas tiene que hacer la política para las personas y por eso yo le pido más implicación y vamos a presentar una moción en este pleno

bai mahaiburu andrea relato compartido

faltaría más usted antes de traer esta interpelación

que le ha facilitado cuanta información ha necesitado faltaría más señora llanos faltaría más lo que no sé es para qué valen esas reuniones

si no hay ningún avance si se sigue pensando lo mismo si se vuelve a traer aquí y se dice que textualmente hemos manifestado lo mismo faltaría más intentamos ser coherentes intentamos ser coherentes y trabajamos desde luego para ello

se nos dice también que digamos si la solución es que el gobierno las adquiera

lo que digo es que hay un derecho de preferencia y que por lo tanto la normativa nos obliga tanto al gobierno

y no creo que usted me esté pidiendo no lo creo señora llanos ya tendremos ocasión seguramente de que nos lo aclare en esa moción que parece que van a presentar

que nos saltemos la ley no sé si esa es la solución que nos proponen yo de momento desde luego no es la que propongo en todo caso habrá posibilidades de modificaciones normativas que se vienen realizando desde este departamento para mejorar en la medida de lo posible la situación de las personas dónde quedan las personas las personas quedan en el centro de nuestra política o intentamos que así sea y cuando hablamos de las personas

es decir señora llanos quién tiene más interés quién está en una determinada situación en un momento dado quién está en una lista esperando

y hablar de las necesidades de las personas es hablar de las necesidades de todas las personas y si esta es la campaña a la que se refiere

en la defensa de las personas y lo intentaré haciendo hasta ahora había pensado que siempre había contado también con la compañía en ese trayecto

a partir de ahora usted decidirá vuelvo a reiterarle que es fundamental comprender que estamos en una relación privada relación jurídica privada ante esta situación desde el gobierno vasco

que podemos hacer como le he trasladado es velar por el cumplimiento de la normativa de vpo es decir porque se cumplan los requisitos el acceso a la propiedad por parte de los inquilinos actuales solo podrá ejercitarse si se dan dos premisas y conviene decirles la verdad en primer lugar que la ute benta berri quiera enajenar

y en segundo lugar que se ejercite el derecho de adquisición preferente y en tercer lugar que se cumplan los requisitos de vpo usted sabe igual que yo

a una vivienda en régimen de propiedad a una vivienda protegida que quizá al de unos cuantos años no cumplirían los requisitos para acceder

solicitud tuviera que formularse en ese momento yo no sé cuál es la situación de cada una de las familias la situación económica lo que quiero es poner encima de la mesa la realidad

como he expuesto nos reunimos el veintiocho de octubre en donostia no fui yo

arrendamiento de las viviendas debe tenerse presente que en el caso hipotético de que quisieran vender las viviendas los futuros compradores como he dicho deberían cumplir con los requisitos en cuanto a la situación de los contratos de los inquilinos actuales y sus prórrogas entendemos que mientras exista voluntad de ambas partes

reconducción por el plazo que estimen oportuno en relación a la imposibilidad de que los inquilinos de benta berri puedan acceder bien

que es el registro que está gestionado por nuestro departamento y que se gestiona conforme a la orden de quince de octubre del dos mil doce y que dice que

en el mismo régimen o en el de compra durante los seis meses anteriores a la fecha de finalización de su contrato

y esto es lo que creemos que debe respetarse eskerri asko aburto jauna

andrea sailburuok legebiltzarkideok este gobierno a través del consejero de empleo

se sacó la semana pasada un nuevo anuncio de la chistera sí que fue un anuncio sorprendente no sabemos si tan improvisado porque fue en el marco de un foro de una intervención en la que el consejero la llevaba preparada en este anuncio el consejero planteaba la posibilidad de

recargo impositivo o un impuesto específico para financiar el coste y la atención de los servicios sociales queremos saber

a plantear en estos momentos una subida de impuestos dirigida a los ciudadanos dirigida a las personas a los ciudadanos vascos

señora garrido una trampa en la pregunta este consejero no ha planteado ninguna subida de impuestos para suplir la deficiente gestión de los recursos públicos dígame dónde está escrito eso no hagan trampas señora garrido

le voy a decir lo que dije textual otro reto de futuro de futuro no del año que viene de futuro de las políticas sociales es el de la financiación del sistema

pero no hemos establecido un modelo de financiación que no genere tensiones al sistema si el dedo señala a la luna señora garrido no miren al dedo

no desaparece hay un problema a futuro con la financiación de los servicios sociales y mire lo que dije hace tan solo un año en el mismo foro en estos momentos el gran reto de los servicios sociales es la financiación del sistema debemos hablar de fiscalidad

si nos comparamos con los países del norte de europa sabe lo que ha cambiado lo único que ha cambiado es que en este caso en este caso los medios de comunicación llevaron el tema a titulares bienvenido sean los titulares si hemos logrado captar su atención

sí señor consejero últimamente los medios de comunicación llevan muchos titulares en relación a cuestiones que tienen que ver con su departamento como el anuncio

para intentar recuperar las cantidades adeudadas a la administración por la gestión de las prestaciones económicas cuando tenemos sesenta y cinco mil trescientos treinta y siete perceptores

el número de cartas que usted va a enviar y el número de perceptores de la rgi

garantizando la sostenibilidad de los recursos públicos y su viabilidad en el futuro y la realidad es que con este anuncio en el que usted decía que existen posibilidades fiscales a tener en cuenta que se puede incidir en una reforma fiscal

es que este gobierno plantea nuevos impuestos para tapar su deficiente gestión en los recursos públicos esa ineficiente gestión en lanbide

más de ochenta millónes de euros en cobros indebidos de los que todavía faltan por recuperar sesenta y nueve millónes y de por los que usted va a enviar esas sesenta y seis mil cartas a las que hacía referencia

que lo tiene sin reorganizar todavía además porque no tiene la rpt aprobado entregado en cuerpo y alma a la gestión de los expedientes de la rgi

no sabemos muy bien cómo calificarlos cuando el objetivo real de lanbide

y personas que están dentro del sistema para tener una oportunidad este gobierno a través de usted señor consejero ha tenido la osadía de proponer más impuestos sin hacer un control efectivo del gasto público parece ser que a este gobierno no le parece suficiente los esfuerzos adicionales que han tenido que hacer hasta ahora los ciudadanos

o un impuesto específico cuando lo que tenía que hacer este gobierno es controlar el gasto corriente

y controlar desde luego la mala gestión del dinero público como es el caso de lanbide este gobierno

y corregir sus propias deficiencias este gobierno desde luego no puede hacer paganos a los ciudadanos de sus fracasos pidiéndoles esfuerzos adicionales a través de nuevos impuestos este gobierno no puede trasladar su responsabilidad porque es su responsabilidad y usted tiene una responsabilidad

a los ciudadanos por no hacer una adecuada y correcta gestión del dinero de todos eskerrik asko garrido andrea aburto jauna zurea da hitza

de trampa en trampa señora garrido de trampa en trampa

al sistema de protección social he hablado de la dependencia y usted lo sabe pero les

se dicen cosas que poco tiene que ver con la realidad poco o muy poco

que porque no las quieran comentar no desaparecen el envejecimiento la demografía el crecimiento exponencial de las necesidades de las personas mayores y para eso es necesario afrontar la situación

hay dos formas unas quienes pretendemos que en el futuro dentro de veinte años este sistema dé

y otros quienes no se lo plantean quizá porque lo que no les importa sea que ese sistema sea recortado porque quienes accedan sean las personas que más recursos tienen le voy a decir algunas cosas que he venido diciendo desde el año dos mil seis

hacen en nuestra opinión impensable el mantenimiento del creciente entramado de recursos sociales

dicho en este parlamento cuando comparecí como diputado en la ponencia sobre la ley de servicios sociales lo puede consultar señora garrido

tres de junio del dos mil nueve sabemos que habrá financiación estatal hasta el dos mil quince en la ley de la dependencia y luego qué solo tenemos

no son excluyentes habrá que abordar en algún momento una respuesta fiscal que obligaría a incrementar la recaudación periódico entre mayores dos mil once

hay soluciones reducir el gasto social priorizar el gasto o aumentar los ingresos y finalmente

que no le pareció tan mal entonces al partido popular necesidad de articular políticas que garanticen los ingresos suficientes se trata de saber qué margen existe para elevar los niveles de presión fiscal año dos mil ocho señora garrido

también recoge nuevas vías para la obtención de mayores ingresos públicos

azalduko dugu egiten duguna la inspección de trabajo tal y como pudieron comprobar en la comparecencia para explicar precisamente las actuaciones

alta velocidad realiza su trabajo de forma profesional minuciosa y antes de que se enciendan

ha reforzado las campañas relacionadas especialmente con el sector de la construcción para atajar situaciones de precariedad y los incumplimientos más frecuentes y graves de la normativa

obras ha abierto expedientes realiza de forma regular campañas especificas de seguimiento

la autovía de gerediaga elorrio el canal de deusto san mames

realiza además actuaciones rutinarias de examen de condiciones materiales de trabajo y seguridad de adecuación a la normativa de prevención de riesgos laborales de verificación de protecciones colectivas del adecuado montaje de las líneas de vid de uso de arneses de la estabilidad de las plataformas elevadoras

consultas sobre la plantilla de cada empresa subcontratista consultas sobre cotizaciones a la seguridad social control del cumplimiento del convenio colectivo examen de documentación verificación de entrega de epis en conclusión la inspección está realizando su trabajo de forma eficaz

la paulatina reducción de accidentes graves y mortales tiene que ver con esta labor

que el aumento previsto de plantilla que les hemos anunciado en el servicio de inspección nos permita seguir avanzando en esta materia y en definitiva mejorar
las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de este país eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hogeigarren puntua galdera

de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia

para la fijación de criterios comunes sobre la acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios mediante una resolución de dos de diciembre

publicó un acuerdo de este consejo territorial donde se fijaba un plazo hasta el dos mil quince para acreditar la certificación del personal

la ayuda domiciliaria en preguntas que le hicimos por escrito a usted nos contestó que estaba llevando a cabo algunas gestiones con las comunidades autónomas

prorrogar ese plazo de llevarlo más lejos y esta es la razón por la que le preguntamos qué frutos han dado esas gestiones hay posibilidades de que ese plazo se lleve más lejos
ya conoce usted los términos de la pregunta quedo a la espera de su respuesta eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

establecido para la acreditación de las certificaciones profesionales de atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y de atención socio sanitaria a personas en el

concluye efectivamente el treinta y uno de diciembre del dos mil quince en la última reunión de la comisión delegada del consejo territorial de servicios sociales se celebró el pasado mes de octubre el día veintinueve exactamente se asumió la posibilidad de prorrogar el plazo establecido para la acreditación

también se acordó convocar una nueva reunión del grupo de trabajo específico reunión en la que se analizarán los datos que desde las comunidades autónomas

de la comisión sectorial la territorial donde nos reunimos los diferentes consejeros y consejeras con la ministra en este caso y es ahí donde se tendría que adoptar la decisión de prórroga pero

las indicaciones o lo que apuntan los indicadores observados en esa reunión

puede ser posible siguen abiertas las conversaciones entre el gobierno y los gobiernos autónomos para llegar a ese acuerdo que posibilite prorrogar el plazo de acreditación de esas competencias adquiridas por experiencia laboral

de los servicios destinados una vez más a la atención a las personas mayores en una situación de dependencia eskerrik asko aburto jauna itxaso jauna zurea da hitza

no es otra más que la inquietud y la incertidumbre que sobre este tipo de profesionales se cierne ese horizonte temporal nos dice que

encuentros se baraja la posibilidad de prorrogar ese plazo

sigue dejando a las personas concernidas dentro de la incertidumbre por lo tanto quisiera preguntarle a ver si su departamento tiene alguna previsión

alguna respuesta para el segundo golpe es decir que no haya prórroga porque esto depende de otros muchos agentes y si en ese caso el departamento tiene previsto

de respuesta a esa falta de porque usted reconocía y le reconozco también su franqueza de que las convocatorias

disfunciones que se estaban corrigiendo y por lo tanto se pretendía lógicamente mejorar esas convocatorias hasta ahora solo ha habido dos que yo sepa dos mil once y dos mil trece

y entonces yo le pido por favor en este instante si tiene alguna respuesta para dar sobre todo para despejar las incertidumbres que se puedan cernir sobre los profesionales de este sector inminentemente mujeres y en qué medida

contrarrestrarse la falta de un acuerdo en esa materia nada más y muchas gracias

señor itxaso la ley orgánica cuatro barra dos mil once de once de marzo que modifica la ley orgánica cinco barra dos mil dos de diecinueve de junio de cualificaciones y de la formación profesional

de común acuerdo con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales dará prioridad a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales relacionadas es decir es necesario el acuerdo eso sí me gustaría transmitir es necesario

será convocado en próximas fechas ya estableció que para las categorías profesionales que no se correspondan con titulaciones universitarias

con las funciones que deban realizar y que estén basados en la cualificación acreditada a través de los correspondientes títulos de formación profesional certificados de profesionalidad

o categorías profesionales similares se dice que deberán acreditar la cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

a personas en el domicilio en nuestro caso y respondiendo a la pregunta que con mucho acierto hacía el señor

en nuestro caso mediante una resolución en este caso conjunta

del viceconsejero de formación profesional y del viceconsejero de empleo y trabajo ya se ha convocado el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales

formación en ciertas unidades de competencia entre las cualificaciones profesionales se abre una convocatoria que permita acreditar la competencia profesional entre esas convocatorias están la de atención socio sanitaria a personas en el domicilio y también

gracias presidenta consejero el gobierno vasco aprobó en enero del dos mil catorce el plan de empleo dos mil catorce dos mil dieciséis

de la juventud para lo que se ha establecido un programa operativo denominado fomento del empleo juvenil garantía joven pasados unos meses

este grupo parlamentario dirigió a la consejera de educación política lingüística y cultura y a usted mismo varias preguntas para respuesta por escrito sobre todos y cada uno de los programas que contiene en plan de fomento de empleo juvenil

pero entendemos que la situación es lo suficientemente preocupante como para requerir que se materialicen las acciones y que se expliquen y puedan visualizarse sabemos que se han convocado varios programas y subvenciones que se ha organizado alguna jornada con empresas privadas

con el apoyo al emprendimiento joven con la formación dual con el talento joven con la primera experiencia laboral

en qué fase de desarrollo se encuentran las acciones correspondientes a las áreas contempladas en el programa operativo destinado al fomento del empleo juvenil eskerrik asko

bai mahaiburu andrea eskerrik asko señora rojo decirle en primer lugar que comparto el cien por ciento de

preocupación del conjunto de la sociedad el plan de empleo dos mil catorce dos mil dieciséis es un instrumento que está dirigido a impulsar las iniciativas públicas más adecuadas para propiciar la consolidación de los empleos existentes en primer lugar la creación

y productivo en segundo lugar y en tercer lugar el aumento de la empleabilidad de la población activa

también es un objetivo de lanbide también y recalco lo de también entre sus objetivos

y la inserción laboral de las personas más desfavorecidas especialmente en este caso de las personas jóvenes así entre los programas operativos que conforman el plan se establece uno específico de fomento del empleo juvenil dotado con veintiocho millónes de euros

son diecisiete iniciativas agrupadas en cuatro ejes de actuación apoyo al emprendimiento joven formación dual primera experiencia laboral y talento joven de las diecisiete iniciativas dieciséis están en ejecución

por lo tanto creemos que mayoritariamente estamos cumpliendo con la planificación prevista eskerrik asko aburto jauna rojo andrea zurea da hitza

señor consejero me alegro que comparta el diagnóstico que hacemos sobre la situación del paro juvenil y de la situación de los jóvenes

pero lo que creemos es que el gobierno vasco debiera hacer algo más que

que ya anunció programas que va a poner en marcha según los últimos datos del informe regional asempleo en lo que tiene que ver con euskadi y el colectivo de menores de veinticinco años en euskadi se han perdido treinta y siete mil cien empleos juveniles un cincuenta y ocho por ciento desde que empezó la crisis

también es cierto que la situación económica no es igual que en otras comunidades autónomas

que están ocupados mientras en el tercer trimestre de dos mil siete había muchos menos de los que podemos decir a día de hoy

juvenil se sitúa en el veinticuatro coma cuatro por ciento creemos que el gobierno vasco no está dando soluciones claras

pero que a la hora de la verdad no tiene iniciativas políticas concretas

unas jornadas organizadas por el gobierno vasco y que casualmente aparecieron ayer publicitadas en un medio de comunicación pedimos y exigimos que sea la juventud

que tengan partidas presupuestarias concretas y que no se disfrace todo ello de una transversalidad que no acabamos viendo en ningún sitio por ello lo que le pedimos al gobierno vasco es que además de hacer diagnósticos ponga en marcha políticas claras de creación de empleo y de programas que lo que hagan es solucionar los problemas y vayan más allá

bai mahaiburu andrea señora rojo creía de verdad que compartíamos algo más que el diagnóstico

está pactado con ustedes por eso digo que creía que compartíamos

el apoyo al emprendimiento joven está dotado con cinco coma seis millónes de euros se desarrolla a través de las siguientes acciones ayudas a jóvenes promotores de nuevas ideas empresariales proyectos locales de emprendizaje convenio con gazte enpresa

jóvenes junior cooperativas acciones innovadoras por el emprendizaje juvenil todas y cada una de las acciones en ejecución y con una previsión de creación de setecientos cuarenta empleos directos segundo eje formación dual

con cuatro coma nueve millónes de euros incluye las siguientes acciones

práctica en centros de trabajo ambas líneas en ejecución en colaboración entre lanbide y el departamento de educación política lingüística y cultura

el tercer eje primera experiencia laboral dotado con cerca de doce millónes de euros se desarrolla a través de las siguientes acciones lehen aukera contratación de jóvenes en empresas vascas en el exterior contratos de relevo

orientación específica a jóvenes todas ellas en ejecución en cuanto al cuarto de los ejes talento joven

dotado con cinco coma siete millónes de euros se ejecuta a través de becas de internacionalización global training apoyo al retorno juvenil

y que tiene una dotación de uno millón de euros creo recordar en el proyecto de presupuestos del año dos mil quince becas de proyecto naciones unidas tres de las cuatro iniciativas por lo tanto

presentaremos los resultados definitivos de las acciones a favor del empleo juvenil con absoluta transparencia así como también el plan de acción de este gobierno para el año dos mil quince y la evaluación completa del plan del dos mil catorce